de un título de transporte de estas características pero también por cuanto fortalece la idea de país y ofrece la posibilidad de unir a los ciudadanos de los tres territorios

de hacerlo fomentando el transporte público lo que además redundará en enormes beneficios desde una perspectiva de movilidad sostenible gaur egun

de acción con lo que se su utilización se circunscribe a dos territorios históricos somos conscientes

entre las soluciones existentes lo que supone que un plan de implantación que las integre tenga que resolver un gran número de problemas a día de hoy el único proyecto

tarjetas entre territorios llevados a la práctica es el puesto en marcha por euskotren o operador multimodal dependiente del departamento de medio ambiente y política territorial

por otro lado la utilización del concepto de billete único puede ser objeto de diversas interpretaciones puede referirse

o a la herramienta para implantar la integración tarifaria o bien que sirva para permitir el uso de las tarjetas de cada territorio en todo euskadi

lo que hace que no esté del todo claro lo que se quiere decir cuando utilizamos la expresión billete único por ello el objeto de disponer información sobre los planes específicos

en relación con la implantación del billete único le realizamos la siguiente pregunta qué previsión maneja su departamento señora consejera para la implantación

aldaiturriaga jauna por una parte la colaboración institucional nos parece imprescindible en este capítulo

territorio histórico al entender que es la única manera de asegurar el éxito del proyecto así el pasado catorce de junio tuvimos la primera reunión de esta legislatura la primera asamblea de la autoridad del transporte de euskadi se estableció ya una ponencia específica en el seno de esta autoridad del transporte para la implantación del billete único aprobada la propuesta de esta ponencia participarán las tres diputaciones

a falta de tener todavía la autoridad del transporte de álava a la par se está trabajando en gipuzkoa con la autoridad del transporte

euskotren está realizando labores de centro compensador y también estamos incorporando de la mano

que creemos que pueden tener una gran potencialidad en nuestras ciudades y en vitoria en particular con esta colaboración interinstitucional queremos evitar problemas como el que surgió en la frontera de

de previsión al no haber tenido en cuenta que las canceladoras de eibar estaban ya adaptadas a barik y por tanto era necesario adaptarlas a mugi firmando previamente

para la compensación de viajes y también para la adaptación de esas canceladoras en lo que se refiere al plan de implantación le diré que estamos trabajando en un master plan para la interoperabilidad entre

donde tenemos que resolver problemas de títulos bonificación de colectivos descuentos de usos tecnología seguridad etcétera otros aspectos este master plan en cuanto lo tengamos ultimado es nuestra voluntad presentarlo en la comisión y

en la que trabajamos la interoperabilidad bat barik es decir

y una segunda fase en la que trabajamos la interoperabilidad ya de las tres txartelas bat barik y mugi la primera parte de la fase primera interoperabilidad de bat barik

una primera en la que se integrarían barik y por parte de bat

entre enero y septiembre de dos mil catorce en la segunda fase tendríamos la interoperabilidad con el resto de modos de álava los interurbanos de araba

el alquiler de la bici eléctrica como decía al principio y este plan nos llevaría desde noviembre de dos mil catorce hasta febrero de dos mil quince y la fase dos que sería la interoperabilidad entre bat barik y mugi se irá implantando progresivamente empezando

incluida la llegada hasta hendaya planificada a lo largo de dos mil catorce

todo el resto de integraciones se iría implantando a lo largo de dos mil quince eskerrik asko eskerrik asko

euren eskubideen urraketak gelditzeko desde euskal herria bildu haremos seguimiento de este acuerdo para que se cumpla lo acordado y por supuesto instamos a este gobierno a que en todos aquellos conflictos laborales que tiene abiertos abandone la vía de los despidos y los ere y apueste

generados en gran parte por una mala gestión por ejemplo no cobrando más de trescientos cuarenta mil euros en alquileres del bizkaia arena

en comprar un graderío de segunda mano pagando el precio como si fuera nuevo

otro graderío en el almacén desde el gobierno no se han pedido responsabilidades de esta gestión nadie ha pagado por esta mala gestión esperamos realmente poder hablar sobre ello en otra próxima ocasión con usted y con aquellos que han sido máximos responsables de la gestión del bec que han llevado a la situación actual

cuya comparecencia pedimos hace más de un mes y seguimos a la espera eskerrik asko

lana sortzeko asmoarekin hainbat ekimen martxan direlarik beraz irakurri besterik ez duzu en cuanto a que va a usted hacer seguimiento del convenio

me parece muy bien pero el seguimiento lo tienen que hacer los trabajadores y la dirección de la empresa que son los implicados directamente que usted lo haga o no lo haga creo que no va a ir a ningún lugar en cuanto a las actuaciones en el bec en el bec hay muchas actuaciones a poner en marcha

la estabilidad para el año dos mil dieciséis y desde luego

sí me gustaría hacer referencia a los puntos del acuerdo que se ha conseguido

en este año a partir del uno de julio del tres coma treinta y tres por ciento y en los años dos mil catorce dos mil quince y dos mil dieciséis del seis coma sesenta y seis por ciento no es menos cierto que a partir del dos mil diecisiete hay compromiso de recuperación por tanto vamos a poner todo encima de la mesa y a cambio de ello se retira el ere de suspensión

presentado por la empresa con el compromiso de no presentar ningún otro ere ni de suspensión ni de extinción para el dos mil trece dos mil diecisiete y para mantener toda la plantilla actual durante todo ese periodo luego tenemos un convenio en marcha

dos personas que sufrieron muy de cerca la violencia terrorista cruzaban por primera vez las puertas de un centro educativo del país vasco

relataron su testimonio ante medio centenar de estudiantes de educación secundaria

con el impacto de haber conocido de primera mano hechos tan dramáticos y capaces de comprender el sufrimiento de los otros esta experiencia con rigor cuidada con trabajo previo y posterior a cada una de las sesiones logró extenderse a más de mil quinientos alumnos en poco más de un curso escolar y fue de manera muy positiva por las direcciones de los centros el profesorado los alumnos y por las propias víctimas educadoras las víctimas que venían haciendo posible

de la experiencia positiva sin embargo hemos llegado a conocer que ninguna víctima ha visitado los centros vascos desde el mes de enero de dos mil trece encuentro este comprometido por el ejecutivo anterior por eso señora uriarte deseo formularle

el criterio de su departamento con respecto al mantenimiento del programa de víctimas educadoras valorado por numerosos centros como una experiencia vital para el alumnado

el criterio de este departamento al respecto ha sido explicito desde el primer día nik esan nuen otsailaren hamaikan sailaren jarduera ildo nagusiak azaltzeko

y así ha quedado recogido en la iniciativa dieciséis

aztertuko dugu así pues la continuidad del programa de víctimas educadoras en las aulas queda garantizada eskerrik asko uriarte

mire sobre las aulas vascas ha pesado durante demasiado tiempo el silencio

ominoso diría yo que impedía que el relato de personas que han sufrido la violencia injusta traspasara sus muros

pero el testimonio de las víctimas fue considerado abrupto durante bastante tiempo

hubo mucho diálogo y muchos recelos para vencer algunos de buena fe otros no tanta

fue el fin fue el compromiso de toda la educación vasca por el respeto a los derechos humanos más allá de cualquier fin o circunstancia para entonces

para entonces se cuidaba la selección y la formación de las víctimas educadoras para entonces

que han desaparecido de su programa garatu para entonces se cuidaba toda confidencialidad con respecto a este programa

y con las familias para entonces se hacía todo esto pero todo esto se ha parado de nuevo

es un tiempo que cientos de alumnos no van a volver a recuperar ellos no lo van a volver a recuperar porque nadie ha hablado con los técnicos del departamento con respecto a esta cuestión nadie en absoluto ha hablado con las víctimas nadie ha sido interlocutor en el departamento es un tiempo

que como le digo no se va a volver a recuperar porque mire usted la escuela

la caja de la memoria y la memoria es justo el tributo que debemos a tantos asesinados injustamente en este país pero además

del proceso es el alumno lo que ocurre es que hay una modificación significativa educativa a favor del alumno el alumno empatiza con el sufrimiento y automáticamente

concluyo pidiéndole que reponga de inmediato este programa y comunicándole mi disgusto porque jamás debiera haberse parado mucho menos en un momento de proceso de convivencia de tanto impacto en este país

señora celaá no considero que en estos meses se haya parado el programa durante estos primeros meses de legislatura

educadoras desarrollado hasta el momento al respecto he de decir que no nos ha resultado nada fácil ya que no ha quedado en el de departamento constancia de ningún documento de evaluación o de balance cuantitativo o cualitativo

atera ahal ditugu señora celaá es el momento de hablar

y posiblemente alguno más es el momento de consensuar las acciones que se vayan a llevar a cabo mirando hacia adelante de cara al próximo curso daremos continuidad a las experiencias educadoras mediante

estos podrán ser según el criterio de cada centro tanto presenciales como escritos o audiovisuales así mismo reforzaremos la información a los centros así como la formación previa al profesorado con el objetivo de mejorar el desarrollo de esta iniciativa

señor gatzagaetxaberria yo supongo que he acertado con el consejero al que le tengo que hacer la pregunta

hace unos días salió diciéndonos que la previsión a la baja de las propias previsiones de este gobierno

que la tasa de paro se iba a maquillar porque otras cerca de treinta mil personas iban a dejar de ser activas

ya sé que ustedes presentaron el plan de reactivación del empleo dos mil trece dos mil dieciséis en el mes de marzo a la vista de estas nuevas previsiones suyas y empeoramiento de las circunstancias

la pregunta que le hemos hecho es si tanto confían ustedes en las medidas del gobierno de españa para salir de la crisis

puntualmente el cuadro macroeconómico que hemos expuesta hace una semana hablaba de una previsión de una pérdida de puestos de trabajo de veinte mil este año

la previsión por el todavía crecimiento de la economía vasca

nuestras predicciones económicas supondría aproximadamente la pérdida de seis mil puestos de trabajo

al fondo de la cuestión mire este gobierno está gobernando los dos documentos básicos de la planificación económica estratégico política el programa de gobierno por un lado

la estrategia enlazándola con la política económica presupuestaria de hecho los primeros meses de este año hemos puesto en marcha el programa de reactivación del empleo hemos puesto en marcha un programa de apoyo financiero a las pequeñas y medianas

hemos puesto en marcha un programa en diferentes segmentos de la demanda y el consumo de renoves y

pero a pesar de todo eso tenemos el objetivo en dos centros fundamentales de la acción político económica que es la reactivación de empleo ver cuál es el problema principal que tiene

y en segundo lugar la búsqueda de la competitividad para eso tenemos también en nuestra política económica usted lo conoce porque hemos hecho público hace unos días el calendario de iniciativas económicas en materia de planificación como es la iniciativa relativa

con la tecnología y la especialización

y en tercer lugar está el tema relativo a la estrategia planificación de internacionalización de la economía vasco por lo tanto le digo hemos tomado estas medidas hemos aclarado el cuadra macroeconómico por cierto con una

le recuerdo que el gobierno central el cuadro macroeconómico con el que funcionaba en materia de crecimiento y de empleo data del mes de septiembre y no se ha renovado hasta el pasado mes de mayo evidentemente se ha puesto de manifiesto que las caída de la actividad económica este año iba a ser tres veces mayor pero este gobierno está gobernando y ahí están las manifestaciones y recejos que la acción que está haciendo este gobierno muchas gracias

muchas gracias señor consejero yo ya sé que este es el gobierno de los planes

ustedes hacen muchos presentan muchos en la prensa aquí no viene ninguno tampoco vino el de reactivación del empleo pero yo le voy a decir que

los datos que ustedes nos han mandado de ejecución presupuestaria a treinta y uno de mayo es decir hace quince días fomento del emprendimiento

ocho millónes de euros previstos disposición de gasto cero

modernización de equipamiento productivo ayudas financieras a la inversión

iniciativas empresariales catorce coma cinco millónes de euros cero

programa de extensión de la innovación al tejido empresarial y programa de innovación y desarrollo empresarial

dinamización comercial comercio todas las inversiones del comercio fomento del comercio

disposición de gasto doscientos noventa y cuatro mil aquí por lo menos algo parece que han hecho

ayudas financieras a la inversión cuatro coma cinco cero

actividad investigadora centros de investigación cooperativa investigación estratégica

zero nos vamos a lanbide

setenta y uno millónes previstos ejecutados de ayudas al empleo ya sabe

ejecutados de setenta y uno millónes seis perdón ejecutados no obligaciones de gasto reconocidas dos y pagados uno de setenta y uno millónes de euros convocatorias de ayudas a la creación y mantenimiento de empleos

cero convocatorias de lanbide programas de compromisos por el empleo acciones de mejora nueve millónes de euros cero

y así podemos seguir con todas las partidas que teóricamente

gracias señora presidenta señor damborenea si usted quiere debatir conmigo sobre la ejecución de política presupuestaria dígamelo lo que no puede hacer

preguntarme sobre las medidas en relación al empleo y luego hablarme de la gestión y el grado de ejecución presupuestaria y yo le daré la explicación pero a pesar de todo

mire la gestión presupuestaria y usted parece que ha confundido y mezcla dos conceptos absolutamente distintos la obligación reconocida con la disposición de gasto y la autorización la puesta en marcha de los programas subvencionales que usted ha indicado y cualquier otro que pueda

bastan simplemente con la autorización para ponerlos en marcha la obligación reconocida es en el momento en que existe un gasto realizado y se procede a la contabilización

que tienen un devenir y un enlazamiento a lo largo del presupuesto a través de unas convocatorias públicas y que tiene un procedimiento largo si usted pretende caricaturizar

enlazándola con el desarrollo la situación del empleo en fin está mezclando cosas distintas interpéleme claramente pero a pesar de todo creo que le estoy contestando
la ejecución presupuestaria va en la medida en que estamos desarrollando medidas de nada más y muchas gracias eskerrik asko gatzagaetxebarria denbora

gracias presidenta buenos días a todas y a todos señor lehendakari

en esta cámara incluye dentro del eje número dos la iniciativa doce

y los derechos humanos dice que los objetivos son renovar y reforzar el compromiso de la policía vasca con los principios valores libertades y derechos democráticos

y contribuir en este nuevo contexto socio político se dice

convivencia y respeto a los derechos humanos se habla de realizar incluso un seguimiento y una evaluación

con estos principios en nuestra opinión la iniciativa

ha perdido su compromiso con los derechos humanos y tiene que retomar un camino que ahora no sigue esto es lo que básicamente se ha entendido por distintos grupos de este parlamento y también por los propios agentes de la policía vasca

ha perdido su compromiso con los derechos humanos y que tiene que retomar un camino que ahora no sigue es decir con esta iniciativa

solo para dar satisfacción a batasuna se le pone en entre dicho se duda de su compromiso

para adaptarse a eso que se dice un nuevo contexto socio político

por eso realizamos esta propuesta porque nos corresponde porque el plan de paz y convivencia en lo que corresponde al gobierno vasco tiene que comprometer a todas aquellas políticas públicas que se vean relacionadas con tal objetivo

en la defensa de los valores democráticos yo sinceramente estoy sorprendido por las interpretaciones que se han hecho cómo vamos a cuestionar el compromiso

cuando en realidad la hemos defendido siempre y a veces en solitario señor maneiro nadie ha cuestionado nada

un servicio público con gran eficacia y compromiso en momentos de terrorismo y lo que décimos es que ahora tiene que adecuar

usted lo ha dicho renovar y reforzar es lo que décimos renovar y reforzar ahora por lo tanto su modelo policial y su servicio público a la ciudadanía se tienen que adecuar a la nueva realidad este es el significado

que presentó la consejera de seguridad en este parlamento esta adecuación en positivo en positivo señor maneiro se refiere a personas

que han sufrido la presión y las consecuencias del terrorismo que merecen el agradecimiento y el reconocimiento de la sociedad y de las instituciones vascas una institución servicio público insisto que en un contexto socio político condicionado por el terrorismo

en un nuevo contexto socio político puede contribuir a una cultura de paz convivencia y respeto a los derechos humanos este es el fondo de la propuesta del plan señor maneiro

señor lehendakari no disimule hemos entendido perfectamente lo que dice esta iniciativa y esta iniciativa

todos sin excepción hemos entendido mal será que ustedes en fin no saben expresarse no hay nada que reforzar

ya está comprometida con los derechos humanos y el respeto al estado de derecho no hay nada que reforzar y ustedes ponen en cuestión

para dar satisfacción a batasuna esta es la realidad para dar satisfacción a batasuna ese es el único objetivo lo ha dicho

esta iniciativa nos deja en entredicho es una falta de respeto

lo ha dicho comisiones obreras no tenemos que renovar nada que no hemos perdido lo ha dicho esan esta propuesta sobra porque ese compromiso lo adquieren todos los ertzainas desde el primer día esta iniciativa está

y no es que la hayamos entendido mal nosotros sino que todos hemos visto claro que esta iniciativa este eje y esta iniciativa concreta se plantea así para denigrar a la ertzaintza con el objetivo final y último

a aquellos señores de allí a eh bildu y a batasuna este es el único objetivo por lo tanto yo le digo que son los cargos públicos de amaiur eh bildu bildu y los dirigentes de sortu los que tienen que recibir cursillos en derechos humanos y en respeto al estado de derecho no

que han realizado un trabajo extraordinario durante largos años y eso es lo que usted tiene que decir en lugar de plantear esta iniciativa por lo tanto esta iniciativa a la ertzaintza injustamente y el plan que ustedes han presentado
a las víctimas del terrorismo y busca falsear la historia gracias lehendakari eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jaunak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro estamos en un nuevo contexto socio político sí o no

un servicio público sí o no tiene un servicio público que adecuarse a lo que es el contexto socio político sí o no

por no reconocer lo que ha sido su trabajo en favor de la paz y de los derechos humanos

sí o no señor maneiro lea el plan

o no lo ha leído o quien se lo ha leído le ha pasado unas notas sesgadas o usted lo ha leído de manera sesgada señor maneiro

el desarrollo de esta iniciativa nuestro objetivo señor maneiro es que este plan se construya desde la participación

en este contexto socio político en el que todos podemos contribuir

jada ezagutzen dugu jokamolde hori las reglas de juego están escritas en alemán

de un comité de supuestos expertos ligados en su inmensa mayoría a la patronal bancaria y de seguros

de las pensiones y de abrir este inmenso y apetitoso espacio a las dentelladas de los fondos privados de pensiones eso lo ha reconocido hasta

con el sometimiento de la cuantía y actualización de las pensiones

factor de equidad intergeneracional factor de revalorización automática pretenden hacernos creer que los futuros recortes en las pensiones

a razones supuestamente objetivas y no a decisiones políticas adoptadas por el gobierno y el sistema

a la oposición sindical y social esan bezala autu argi

milaka milioi eurorekin es preciso señalar que la actual reforma impulsada por el gobierno del partido popular

de la iniciada por el gobierno del partido socialista en dos mil once que supusieron en su momento ya la elevación de la edad de cotización a sesenta y siete años y el empeoramiento de las bases de cálculo de las pensiones con la regulación entonces del llamado factor de sostenibilidad se abrieron las puertas a esta nueva y brutal ofensiva

erantzun nahi dut me pregunta usted por las medidas que propone el gobierno

en todo caso yo creo que conocerá usted la propuesta que en el marco de las conversaciones derivada en la mesa de formaciones políticas que convoqué en lehendakaritza el pasado veintiuno de mayo se estén produciendo

conozca usted no sé si en ese marco de relaciones entre los partidos políticos en lo que pueda ser la propuesta que desde el gobierno también hemos aportado le interesará o no pero en todo caso le aseguro rebatiendo también a lo que pueda ser

compañero suyo o de alguna de sus coaliciones en esta misma semana hablando del árbol y de los bosques espero que para usted esa propuesta que nosotros hemos realizado no se plantee como una cuestión del árbol que

este gobierno ha mostrado su desacuerdo con las conclusiones del informe de expertos sobre la reforma del sistema de pensiones tal y como usted lo ha reconocido

de transferir a euskadi la competencia en esta materia la gestión económica de la seguridad social y quiero subrayar en este momento ante usted que la descentralización y la transferencia de la seguridad social será en todo caso

del convenio por el que el estado traspase a euskadi dicha gestión posibilidad o eventualidad señora arrondo que como es patente ningún gobierno español ni partido socialista obrero español ni partido popular han querido abordar hasta ahora en más de tres décadas de estatuto

a pesar de que han reconocido que no es inconstitucional lo que planteamos desde

señora arrondo insisto por lo tanto en que una gestión autónoma vasca de la seguridad social es estatutaria es legal es perfectamente posible en ese trabajo permanente estamos y no tengo ninguna duda de que sería mejor

y eficiencia como se ha demostrado defendemos en todo caso señora arrondo un sistema público de pensiones un sistema justo que garantice el bienestar de las personas mayores mediante unos ingresos económicos suficientes seguiremos por lo tanto en ese trabajo

un árbol ante lo que es el bosque de lo que es el sistema de pensiones pero cada ejecutivo de hacer en cada momento aquello que legalmente puede hacer algo que su partido su coalición ha comprobado y está también practicando a velocidad de vértigo allí donde

en todo caso señora arrondo le invito a que así como con pronunciamientos favorables al concierto como los que he podido conocer esta semana desde sus filas

y que hagamos comprometerse a los partidos que hasta ahora se han negado al cumplimiento del estatuto

en que desde lo que ha sido la acción de los gobiernos liderados por el partido nacionalista vasco se ha planteado en su momento también

creo que es importante esta referencia para saber el compromiso también del gobierno vasco

las iniciativas propias en materia de pensiones y vamos a seguir

en esos árboles que ustedes algunas veces subestiman que desdeñan muchas veces y que sin embargo con su colaboración podríamos hacer también para que

lehendakari jauna reclamamos para euskal herria plena soberanía en materia de pensiones y seguridad social no queremos seguir dependiendo

a los más reaccionarios intereses de la banca y las finanzas europeas

recortes sociales y destrucción de derechos pasando además por encima de nuestras mayorías propias

y sindicales reclamamos soberanía para poder construir nuestro propio sistema público de pensiones asentado sobre parámetros de solidaridad

y prestaciones mínimas como el que nos quieren aprobar y fondos privados para los pocos que puedan pagarlos sino de pensiones

señora arrondo cuando se trata de defender las pensiones de defender las competencias estatutarias a las que he querido hacer alusión en mi intervención anterior porque creo que es clave de defender también nuestro concierto económico como también me he referido lo único que a algunos se les ocurre es una palabra

anterior que llevamos treinta años conociendo dos modelos uno el que hace y otro el que habla pero no hace en todo caso

criticando desde la barrera al resto de grupos políticos emplazando a quienes tengamos responsabilidad de gobierno en cada momento y

instalados en los conceptos abstractos y las palabras rimbombantes como ha sido en su intervención anterior

lan egin porque cada vez que abordamos cuestiones concretas tangibles cuya gestión o responsabilidad supera el marco competencial del gobierno y esta es una cuestión también que hay tener presente la izquierda abertzale nos acusa

y se abona al debate teórico pero nunca aporta soluciones mire señora arrondo lo que pueda ser nuestro compromiso también en materia social y por lo tanto también en materia de pensiones

son más de treinta años trabajando con un estatuto sin duda incompleto pero la comunidad autónoma de euskadi con sus sucesivos gobiernos y con los diferentes partidos políticos que han participado en los mismos ha sido pionera en el desarrollo de políticas sociales

el sistema sanitario el sistema educativo antes he hecho referencia a lo que es el ingreso mínimo de inserción hoy la renta de garantía de ingresos para atender a las personas sin recursos

creo que es importante esta referencia porque una cosa es que euskadi no haya podido asumir una competencia que le corresponde

e injusticias históricas del sistema de pensiones en concreto de las pensiones no contributivas especialmente las pensiones de viudedad y se lo pongo como ejemplo de lo que es

insisto en los primeros años de la pasada década por ejemplo fueron las diputaciones forales las que tomaron la iniciativa con un régimen de complementos a estas pensiones no contributivas y fue después el gobierno vasco quien garantizó unos ingresos mínimos a esas personas con la exención

renta de garantía para alcanzar unos ingresos mínimos es decir

del total hemos estado siempre allí donde se juega cualquier derecho cualquier servicio o prestación a la que tenga derecho o pueda beneficiar a la ciudadanía vasca y vamos a seguir reclamando

seguridad social es nuestro derecho y lo vamos a continuar defendiendo mientras tanto señora arrondo no nos vamos a quedar cruzados de brazos vamos a seguir en ese trabajo en favor del concierto de las pensiones de la renta de garantía de ingresos

pues bien voy a finalizar mi intervención con la ratificación de un compromiso

una ley pionera en el estado este es nuestro compromiso con las personas en euskadi todas las personas incluidas las pensionistas tienen la garantía de una pensión mínima algo que usted debería reconocer y poner en valor en lo que es el compromiso de gobiernos anteriores y de este gobierno liderado por el partido nacionalista vasco besterik ez eskerrik asko

lehendakari permítame que inicie esta intervención

una policía integral surgida del pueblo vasco y que lucha contra todos los delincuentes

agrupados entorno a unas siglas así definía su compañero de filas presidente de esta misma cámara y consejero de interior del gobierno vasco juan mari atutxa a la ertzaina déjeme también que haga un repaso sobre la actitud en este país y su impecable recorrido hasta hoy

con un etarra para entonces juan mari atutxa había comunicado a eta que no tenía dinero para pagar el mal llamado impuesto revolucionario

una de las cuales dirigía el miembro de la mesa nacional de herri batasuna

ya lo saben en esta tierra hay quien no perdona pero la policía vasca ejerce su capacidad va ganando enteros

van adquiriendo forma utiliza por primera vez en nuestro país el video como elemento de prueba ante los jueces comienza a desarrollar un modelo de coordinación con la policía francesa da resultados positivos

pedrito de andoain la ertzaintza descubre una fábrica de armas de eta en francia al mismo tiempo en paralelo

policía dispuesta a eso a perseguir la delincuencia con o sin siglas

que para eso está la presión es cada vez mayor en la calle los agentes son blancos ya de la kale borroka y sufren palizas para entonces eta ya había asesinado al superintendente juan carlos díaz arkotxa y luego

casualmente este asesinato vino precedido de una larga campaña de hb contra él otra vez desde entonces hasta hoy

y hoy precisamente hoy después de algo más de treinta años después de todo lo que les he relatado y mucho más ver que en un documento sobre paz y convivencia ustedes mismos los impulsores de esta policía integral tengan tan poca sensibilidad

en un nuevo contexto me deja francamente helada

reconózcame si cree o no que hay una falta de sensibilidad enorme en la inclusión de este capítulo

dónde queda la sensibilidad el respeto de su gobierno a un cuerpo que ha sido tan vilipendiado

cuyos miembros han pasado media vida laboral cubriendo sus rostros cuyos agentes debían cambiar su domicilio para proteger a sus familias

que uno de los objetivos del plan de su gobierno sea que la ertzaintza contribuya a consolidar una cultura convivencia y respeto a los derechos humanos cuando no ha hecho otra cosa

aquello que está directamente en sus manos para contribuir a la paz y a la convivencia es necesario que recordemos lo obvio

los derechos y las libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas y garantizar su seguridad ante cualquier modalidad de delincuencia y no entendemos

un plan como el suyo su plan confuso difuso una especie de coctelera a la que arrojamos todo tipo de ingredientes sin ningún criterio

eso es lo que le vengo a que por favor nos aclare el plan ha sentado mal no a nosotros que también

pero cómo no les va a sentar mal si lo que hace es arrojar dudas sobre ellos

si les están pidiendo un compromiso que ya tienen adquirido desde el minuto cero desde el momento en que reciben su título y visten ese uniforme es como pedirle al periodista compromiso con la verdad de lo que escribe

o al médico compromiso con la salud y la vida de sus pacientes el plan de paz y convivencia debe ser una herramienta para el entendimiento entre vascos pero con mimbres sólidos los mimbres de la verdad y de la justicia el plan de paz y convivencia

fundamentales para la democracia el plan de paz y convivencia debe entenderse como una contribución real

y como un instrumento válido para hacer justicia reparar a las víctimas y cerrar heridas las de una sociedad que mira al futuro con más

esto es mucho más sencillo la historia es que la izquierda abertzale no quiere asumir sus responsabilidades

solo con la apuesta en valor de nuevas instituciones y de los valores democráticos y solo con un relato sincero

es posible construir con pilares consistentes el futuro

y esa tarea que tenemos por delante los vascos necesitamos un plan de paz

que por muy dolorosos que sean son mucho más sencillos llamemos a las cosas por su nombre trabajemos por esa euskadi avanzada

una institución que es símbolo y referente del país vasco democrático como lo son otros símbolos a no ser que el objetivo último de involucrar a los ertzainas en el plan de paz sea contentar al mundo de batasuna

aplacar así su beligerancia histórica con los cuerpos policiales y ahora lo que hacen es poner en solfa

y pedirles un compromiso que ya han asumido con creces desde su despliegue en mil novecientos ochenta y dos integral de la comunidad autónoma vasca plan de convivencia sí pero sujeto a la verdad y a los valores democráticos y libre de ataduras de batasuna que son los que nos cortan el paso y nos impiden avanzar

una policía integral surgida del pueblo vasco y que lucha

estén o no agrupados en torno a unas siglas ese fue el espíritu con el que nació uno de los símbolos de la euskadi democrática

por lo que han pasado lo que han sufrido por lo que han contribuido al fin de eta qué pensarían

manuel irujo jesús maría leizaola juan ajuriaguerra de su gobierno

hacia un cuerpo un símbolo por el que tanto pujaron y lucharon
gracias señora presidenta eskerrik asko

mire en lugar de referirme a las palabras del ex consejero de interior

javier de landaburu de juan de ajuriagerra voy a tomar

en su interpelación escrita quiero aprovechar esta oportunidad señora quiroga para agradecer las palabras que como presidenta

quiero reconocer el valor que tiene escuchar o leer en mi caso el texto de su interpelación la siguiente frase el compromiso de la ertzaintza con los derechos humanos es y ha sido firme

integral vasca hasta el día de hoy su labor impecable en el ejercicio de sus funciones como policía sustentada en principios valores

ha sido desarrollada con ejemplaridad a pesar de haber sido uno de los uno más de los colectivos castigados por el terrorismo de eta y quienes le apoyaban

esta afirmación me congratula haberla leído de lo que es su planteamiento de interpelación escrita a la presidenta del partido popular vasco estoy convencido de que la ertzaintza como institución señora quiroga

se sentirán plenamente identificadas con esta afirmación

presidenta del partido popular del país vasco ha merecido la pena su intervención simplemente por esto por haber leído esto que usted dice

proposamen hau quiroga andrea señora quiroga el gobierno ha hecho una propuesta y ha ofrecido un plazo de tres meses para recibir aportaciones

qué empeño con que queremos complacer a batasuna que queremos contentar a batasuna o a la izquierda abertzale y para esto nos pasan por el morro la referencia

del que reconocemos todo lo que ha sido su trabajo y planteamos el renovar y el reforzar su compromiso y así está escrito señora quiroga

qué empeño qué empeño cuando además

para que luego venga la izquierda abertzale esta misma semana estos días pasados y nos diga lo contrario bueno pues el plan de paz y convivencia tiene una vertiente interdepartamental que integra

para superar lo que creo que a algunas formaciones políticas está afectando en esta cámara y es el vértigo a lo desconocido

algo que la mayoría de los que estamos aquí todos y todas

en un clima condicionado por el terrorismo por la violencia el plan otorga un papel a la ertzaintza como otorga un papel a la universidad a los centros educativos

insisto en la referencia en mi intervención anterior en la respuesta al señor maneiro la pregunta que yo me hago es qué hubiera ocurrido si en este plan no se hubiera ofrecido

como servicio público que es renovar reforzar

sociopolítico como es el actual estoy persuadido de que si no hubiéramos hecho ninguna referencia se habría criticado se habría interpretado

o un olvido imperdonable no no señora no

no señora quiroga estoy seguro de que desde el propio colectivo de la ertzaintza habrían reclamado también como servicio público del que es responsable este gobierno el que se contemplara esa institución como una institución coadyuvante como lo ha sido en favor de la paz y en el respeto a los derechos humanos

para lo que pueda ser un ejercicio de convivencia desde lo que es su renovación y reforzamiento en el ejercicio en los valores

y que insisto alguna vez o muchas veces nos ha tocado en solitario al partido nacionalista vasco defender por eso mi agradecimiento a lo que es

planteada por escrito lo he dicho anteriormente y lo reitero la ertzaintza merece un papel propio y específico dentro de este plan en un momento histórico como el actual de la misma forma que ha tenido su papel de servicio público anteriormente en otro contexto

apuntan a lo que es un vértigo ante lo que es un camino

desgraciadamente en toda nuestra existencia creo que lo que estamos haciendo

una forma de reconocimiento a la labor realizada es una forma de reconocer la importancia del trabajo realizado y de subrayar la proyección al futuro de este papel tan importante este es el espíritu de la propuesta señora quiroga pero insisto una vez más en que se trata de una propuesta

literalmente lo que dice el plan en relación a esta iniciativa que es la número doce de todo el plan de paz y convivencia de toda la propuesta una característica fundamental

y que se construya mediante una metodología participativa de sus integrantes esto se dice en la propuesta

hablamos de elaboración interna y de una metodología participativa

permítame maliciosa se ha sacado el texto del contexto para tratar de que dijera algo que no dice algo que en cualquier caso

no por mucho que usted pretenda hacer este ejercicio precisamente ante un gobierno del partido nacionalista vasco

la atención en esta institución porque escuchada su interpelación

su interpelación la pregunta que cabe hacerse es

y no ocurre lo mismo cuando hablamos de las universidades las escuelas o los medios de comunicación públicos que también están mencionados explícitamente en el plan he defendido siempre siempre el papel de la ertzaintza y de las personas que han formado parte de esta institución

y lo he subrayado en esta cámara en mi anterior intervención y en unas cuantas intervenciones

cuando me ha correspondido otra responsabilidad de la misma forma he defendido siempre el papel de la universidad o el de los centros educativos

iniciativas legislativas en legislaturas anteriores en relación a la memoria de las víctimas del terrorismo por ejemplo y que se contemplan también en la ley de víctimas del terrorismo

esta convicción ha sido siempre plena y lo es ahora en mayor medida

lo que yo siempre he defendido me alegro de que estemos en el mismo camino beraz

gracias señora presidenta lehendakari voy a empezar por algo que me parece que es de justicia y que yo no le puedo permitir

en el tono en el que usted ha empleado

que se alegra que compartamos esa definición de la policía vasca no juegue con eso

la policía vasca desde su inicio y nosotros no hemos estado de acuerdo con los responsables políticos y las decisiones políticas que se tomaban pero jamás

a que venga aquí hemos puesto en solfa o hemos denigrado de alguna manera al cuerpo y lo sabe

no voy a pasar entre otras cosas porque llevamos años siendo defendidos y escoltados por ertzainas por ahí no voy a pasar señor lehendakari

por supuesto que compartimos esa definición y por eso no entiendo no comprendemos que en este plan de paz y convivencia se dedique una ficha como dice usted una ficha de ese plan

no lo entendemos no lo comprendemos y es que después de escucharle a usted menos todavía cuál es el compromiso que tiene que adquirir

servicio público en este plan de paz y convivencia

es que usted sabe que no es baladí la inclusión de la ertzaintza en este plan y lo sabe y lo que dice

es renovar y reforzar el compromiso de la ertzaintza con los principios valores libertades y derechos democráticos

pero si esto es mucho más sencillo si usted sabe que estos señores no quieren ni una sola policía ni una

y para qué para recibir su portazo para qué para qué han puesto en duda la profesionalidad

esa es la grave irresponsabilidad eso es lo que no comprendemos a estas alturas en la decisión suya porque es su plan de paz y convivencia de incluir esta ficha como si fuera algo en fin que tampoco tiene importancia

le he leído le he explicado cuál ha sido la historia de la ertzaintza

desde su creación en democracia con todas las garantías y ahí han estado y ahora venimos en el dos mil trece a decirles

y que ahora sí tienen que estar alineados con el nuevo tiempo y con el respeto a los derechos humanos es

tan injusto señor lehendakari yo le emplazo a que abordemos este nuevo tiempo

y lo abordemos sin tener encima ningún condicionamiento

sin que nos condicionen pongamos nosotros las reglas del juego las reglas democráticas ese ético mínimo democrático que fuimos capaces de acordar entre todos y a partir de ahí hablemos señor lehendakari

es nuestra institución democrática no necesita hacer ningún reciclaje ninguno

la paz y la convivencia en euskadi se tienen que construir

la justicia y los principios democráticos muchas gracias eskerrik asko quiroga andrea erantzuteko lehendakari jaunak dauka hitza

señora quiroga me dice que no les quiera llevar yo por ahí

del colectivo de la ertzaintza he denigrado yo a la ertzaintza cuando he hecho la referencia textual

yo me refiero a su concepción de policía integral bienvenida sea señora quiroga a esa interpretación de lo qué es policía integral la ertzaintza

después de treinta años de todas las piedras en el camino que han puesto ustedes desde el gobierno español en legislaturas anteriores y en la presente también

no me quiera usted llevar a mí por su camino en una acusación como que el partido nacionalista vasco sea precisamente

no señora quiroga todas y todos sabemos aquí todos muy bien cuál ha sido la responsabilidad en que la ertzaintza pudiera ejercer como policía integral

y en favor de los derechos humanos todas y todos sabemos quién ha hecho

desde el primer minuto hasta este momento en esa labor de ser

pero señora quiroga si usted misma y también en la intervención anterior hemos hecho referencia a dos verbos renovar y reforzar cómo entendemos renovar y reforzar cómo entendemos renovar que no es

sino que estamos hablando de un contexto sociopolítico diferente señora quiroga

usted me hace referencia al suelo ético de la ponencia de paz que todos

en esta legislatura no están presentes en la ponencia de paz y convivencia en este parlamento señora quiroga todavía el partido popular y ustedes están condicionando todas la acción que todos podamos hacer a favor de la paz y de la convivencia todo podamos hacer y debamos hacer

sí señora quiroga podría decir que están poniendo ustedes en cuestión el trabajo que todos debemos hacer

por una cuestión política de enfrentamiento entre dos formaciones políticas o dos sensibilidades ideológicas estamos hablando de algo que transciende a lo que son sensibilidades ideológicas

el propósito de esta iniciativa señora quiroga es reconocer el trabajo realizado por la ertzaintza

y a las personas que la componen el reconocimiento y el lugar protagonista que merecen hau da gure nahia eta beharrezkoa balitz hitzez hitz

en este momento cuál es la base del plan las iniciativas que estamos proponiendo están en consonancia plena con lo que recomiendo las instituciones de mayor prestigio mundial

el manual de la oficina del alto comisionado de derechos humanos de las naciones unidas sobre normativa y práctica de los derechos humanos para la policía

el código europeo de ética de la policía o las recomendaciones también de amnistía internacional nadie está cuestionando nada porque la mirada está puesta en el protagonismo de la propia ertzaintza

compartida que propone este plan su colaboración

que tiene tres meses de tiempo para que pueda recibir sus aportaciones

sigue siendo más necesaria que nunca o sigue siendo necesaria sigue siendo imprescindible espero contar también por lo tanto con lo que es la aportación de la propia ertzaintza bien leído lo que es este plan de paz y convivencia eskerrik asko

gracias presidenta lehendakari parece que en los últimos tiempos crecen las voces

parece ser que upyd no está tan solo como parecía en esta reivindicación a favor de la igualdad y de la solidaridad recuerdo que

a lo injusto del concierto económico y a lo injusto del cálculo del cupo

que un parlamentario vasco dijera en esta cámara que el concierto económico

como ustedes saben perfectamente bien y todos los que están aquí sentados saben perfectamente bien supone un privilegio económico para determinados ciudadanos frente a los restantes que son los paganos de esos privilegios nosotros teníamos claro desde que fundamos el partido en el año dos mil siete

así me lo explicó en su momento el concierto económico y el cupo vasco

y no va a superar la crisis económica ni va a superar la construcción europea

y por eso crecen las voces de diferentes representantes institucionales o representantes políticos

que el concierto económico y el cupo vasco es un privilegio que nos sobrefinancia respecto al resto de los ciudadanos españoles es perfectamente comprensible que los partidos nacionalistas o incluso los partidos conservadores defiendan los privilegios seguramente está en su propia naturaleza al fin y al cabo sabemos que los partidos conservadores siempre han defendido determinados privilegios

nacionalistas siempre quieren conseguir privilegios para tener

políticos y beneficios económicos por tanto es relativamente normal que los partidos nacionalistas y también los partidos conservadores defiendan este privilegio

y defienda el mantenimiento del concierto económico y del cálculo del cupo es una absoluta contradicción uno no puede ser denominado y a la vez defender el concierto económico y el cálculo del cupo y alguien tiene que estar aquí para decir tal cosa e incluso en el parlamento vasco

la controversia se alzan las voces también dentro de euskadi

y fuera de euskadi de manera más pública que efectivamente dicen y ponen este hecho cierto encima de la mesa los mismos que en privado te dicen

aparecen en determinadas ruedas de prensa con cara de disgustados clamando por el mantenimiento del concierto económico así es la política verdad lehendakari

claramente si usted está a favor de la igualdad

si está a favor de la solidaridad o no está a favor de la solidaridad si está a favor de los privilegios o no está a favor de los privilegios si usted

pero no son capaces de reconocer que existen también determinados privilegios que supuestamente nos benefician a los vascos estas son las preguntas que yo le quiero

tiempos se ha puesto encima de la mesa esta cuestión nosotros lo defendemos abiertamente desde el año dos mil siete nosotros lo décimos usted lo sabe bien esto mismo aquí

en san sebastián en pamplona en barcelona en madrid y en cualquier parte de españa esa es la coherencia que nos distingue

nacional que existe a día de hoy y que defiende los mismos principios en todos los lugares

este debate en el parlamento obviamente este debate no lo ha abierto

pero sí que se ha puesto de manifiesto en estas últimas semanas que efectivamente ellos también saben que existen

determinados privilegios y no solamente me refiero al concierto económico sino también al convenio navarro por cierto el señor navarro

querían también privilegios querían un pacto fiscal como los ricos que no quieren pagar impuestos para beneficiar del conjunto de los ciudadanos como los ricos querían un pacto fiscal para pagar menos para aportar menos a la solidaridad y de momento se les ha dicho que no

a un pacto fiscal y ellos qué han dicho ellos han dicho lo natural ante esta situación cómo los vascos sí los navarros sí

los socialistas catalanes tampoco creen en la igualdad de hecho ellos han propuesto un estado federal asimétrico

tengan unos privilegios un segundo nivel donde haya otros ciudadanos con algunos menos privilegios y luego el resto que serían los paganos de esos privilegios por lo tanto

pero han puesto encima de la mesa otra vez este debate tan interesante que no es otra cosa que si defendemos la igualdad o si apostamos por mantener determinados privilegios ya digo no quiero citar a ningún portavoz de esta cámara pero podía

representantes de este parlamento representantes y portavoces han dicho en determinados debates públicos en determinados

como por ejemplo nosotros no queremos la independencia ya tenemos el concierto económico

un representante del partido popular u otro representante del partido socialista cuando dijo hace

en radio euskadi sentado junto a mí qué es lo que dijo este portavoz qué es lo que dijo a día de hoy gracias al concierto económico

al resto de los españoles esto es lo que dijo este portavoz en un medio público de comunicación y en abierto hombre no parece que esto sea muy solidario

venga a sentirse orgulloso de que los ciudadanos vascos nada a la solidaridad del resto de los españoles no parece muy solidario ya digo alguien tiene que estar aquí señor erkoreka para plantear este debate aquí con lo complicado que parece que es pero nosotros no tenemos ningún problema yo no tengo ningún problema hay quien a veces me dice hombre

será complicado no es complicado cuando se defienden principios en los que uno cree es muy sencillo criticar los privilegios es muy sencillo

están todos los argumentos encima de la mesa defendemos la igualdad dentro de euskadi dentro de españa y dentro de europa

más ricos de europa aporten fondos para la solidaridad y para financiar aquellos países más pobres de europa obviamente sí

esa es la igualdad estamos de acuerdo con que las comunidades autónomas más ricas de españa aporten a la solidaridad a las comunidades autónomas más pobres ustedes no ustedes los setenta y cuatro parlamentarios aquí sentados

nosotros creemos en la solidaridad creemos en la igualdad por eso esto nosotros lo defendemos

lo defendemos en euskadi y lo defendemos en cualquier parte de españa y porque además este sistema

se va a acabar cómo se va a acabar primero porque hay aquí

pero mucho más importante que eso saben ustedes lo que es la crisis económica por ejemplo efectivamente las comunidades autónomas que peor lo están pasando

oiga que aquí hay una comunidad autónoma que no aporta absolutamente nada a la solidaridad algo habrá que hacer tanto que defendemos un país

que es europa europa no va a permitir regímenes fiscales de este tipo no los va a permitir en absoluto si creemos en una europa sin fronteras interiores igualitaria solidaria esto no va a tener cabida si estamos hablando de que hay que defender en europa

de naturaleza semejante al que usted ha traído hoy en la cámara numerosas ocasiones usted defiende

hemos tenido oportunidad de debatirlo usted fue a las elecciones forales con ese proyecto político

usted sacó en los tres parlamentos forales en las tres juntas generales cero junteros el proyecto político de upyd que usted tiene toda la legitimidad democrática para defenderlo tiene cero junteros de ciento cincuenta y tres

pero es un proyecto político que no tiene atractivo en la sociedad vasca

pero su proyecto político con el que usted hace sus planteamientos

tiene cero junteros cero concejales y el único representante del partido unión progreso y democracia en todas las instituciones vascas de los miles de representantes políticos es usted que tiene la representatividad y la legitimidad de haber sido elegido por álava bien

pero la gran mayoría de la sociedad vasca de los partidos políticos no están en esas tesis pero usted tiene

discrepo como comprenderá absolutamente de los posicionamientos que usted ha expuesto y nosotros defendemos la existencia del concierto económico y le voy a dar diferentes razones en primer lugar abordándolo por su origen por su naturaleza reciente no voy a entrar en la historia

de la actualización de lo que la adicional de la constitución habla de que se amparan y respetan los derechos históricos de los territorios forales así se dice se amparan y se respetan a continuación viene

que dice que la relación tributaria de euskadi con el estado será a través del sistema de concierto económico bien para que usted entienda la trascendencia del estatuto de gernika el estatuto de gernika tiene una triple legitimación democrática

de obtener una mayoría de los representantes parlamentarios del país vasco que lo negociaron

tendrá que obtener una mayoría absoluta en esta cámara segundo punto de legitimación democrática hace falta también la mayoría absoluta en las cortes generales en las dos cámaras al tratarse de una ley orgánica y tercer punto de legitimación democrática el refrendo popular en la sociedad vasca

para modificar y hacer desaparecer el concierto económico segundo aspecto

por la bilateralidad por el pacto la legitimación democrática vasca no puede imponer

el estatuto de autonomía pero tampoco el estado puede imponer a euskadi esa organización y esa autonomía porque está sujeto al refrendo del pueblo vasco y el pueblo vasco puede rechazar

ese es el cauce ese es el marco en el que hay que entender

entrando ya en lo que es propiamente un régimen tributario es un régimen tributario general que regula la imposición directa

y funciona a través del riesgo unilateral porque cuando usted habla de sobrefinanciación no existe sobrefinanciación nosotros podemos modular en los grande impuestos directos la presión fiscal que queremos fiscal que queremos tener

o menos financiación en función del grado de la modalidad

desarrollemos las facultades normativas que tenemos en imposición directa más o menos

riesgo unilateral si ejercemos una política tributaria

que no den suficiencia podemos tener insuficiencia evidentemente y si tenemos una política tributaria distinta podemos tener más financiación que lo que tienen otros

como le digo de la disposición adicional de la constitución y el pacto del estatuto que se desarrolla luego por una ley de cortes que se llama la ley del concierto económico es así como funciona es así por lo tanto primer lugar hacerle referencia al tema de la solidaridad

de un modelo de riesgo compartido es unilateral para afuera y es compartido para adentro entre ayuntamientos diputaciones y gobierno vasco dependiendo de nuestro sistema la financiación que dé el riesgo de lo que podamos contemplar en el ejercicio de nuestras competencias y su financiación depende de nosotros mismos el estado nunca va a venir en auxilio de las instituciones vascas como no está viniendo en auxilio de los ayuntamientos vascos

cuando hay problemas de financiación en los mercados de capitales somos nosotros mismos es que son las reglas de juego que hemos pactado entre las instituciones vascas y el estado

me hablaba usted de la igualdad de la solidaridad y de los privilegios y de que esto no tiene futuro en la unión europea bueno todo eso con todos los respetos dicho señor maneiro se le desmonta a usted

la unión europea tiene dos sentencias la de septiembre del dos mil seis y la de septiembre del dos mil ocho donde admite perfectamente

que regula con carácter general la imposición en un territorio de la unión europea

la sentencia donde avala la posibilidad de existencia de regímenes tributarios con carácter infraestatal en la sentencia sobre el caso azores septiembre del dos mil seis y sobre la prejudicial que se planteó por unas comunidades colindantes en relación a la validez también y

del concierto económico por el tribunal superior de justicia dos pero es más señor maneiro

constitucional español pues yo le voy a recordar que se lea las ocho sentencias de abril del dos mil doce donde se dice

del principio de igualdad del artículo dos de la constitución dos no hay conculcación del artículo ciento treinta y ocho ciento treinta y nueve

entre territorios de comunidades autónomas y tres no hay conculcación del principio de solidaridad sabe quién dice eso el tribunal supremo de españa en ocho sentencias

esas son las reglas del juego usted legítimamente quiere cambiar aquí no tiene mayoría suficiente para cambiar el estatuto de autonomía en las cortes usted podrá ir ahí pero no olvide una cosa

si fuera así si tuvieran ustedes esa pretensión de querer derogar el estatuto de gernika o la ley del concierto económico no lo podrían hacer también

hay que seguir un procedimiento y ese procedimiento exige la bilateralidad porque está en la naturaleza del acuerdo del convenio la naturaleza paccionada

esos son los elementos nucleares con los que funcionamos ni hay privilegios porque eso está en el marco que le he dicho ni hay infracción de la solidaridad ni hay infracción de la igualdad y le voy a poner un ejemplo patente

el mecanismo que tiene el sistema institucional español para abordar la solidaridad entre territorios está regulado y bien articulado que se llama el fondo de compensación interterritorial

como carga no asumida aplicándose el índice de imputación se aplica el índice de imputación a la cuantía que el estado las cortes determinen en cada momento y nosotros aportamos desde euskadi

lo que el estado diga ahí está la solidaridad y sabe usted a día de hoy cómo contribuye euskadi al fondo de

para buscar ese equilibrio territorial ayudando y aportando a diez comunidades autónomas algunas de las cuales están por debajo del objetivo uno y otras habiendo superado el objetivo uno están en el periodo

en este momento euskadi supone el seis coma veintiuno por ciento del producto interior bruto de la economía española y euskadi aporta

el seis coma veinticuatro por ciento de todas las cargas que corresponden a competencias del estado que no son desarrolladas

de que se respeta la igualdad se respeta la solidaridad y los privilegios económicos por todas las consideraciones y argumentos

sí gracias presidenta señor gatzagaetxebarria cada vez que usted y yo discutimos me recuerda que

y que no tenemos concejales y que no tenemos junteros

están cambiando yo tampoco les deseo a ustedes ningún mal en fin podemos echar la vista atrás

la importancia que ha tenido el partido nacionalista vasco para la gobernabilidad del país y para conseguir determinadas cosas para beneficiar a los suyos durante los últimos tiempos bueno esto igual se acaba esto igual se acaba señor gatzagaetxeberria

y resulta que para poder cambiar la constitución española y para poder cambiar todas las normas injustas y para poder cambiar el estado autonómico igual ya ustedes en fin no pintan nada en las próximas elecciones generales o dentro de poco en los próximos presupuestos vamos a ver las cosas que ocurren en españa a partir de ahora y vamos a ver cómo evoluciona también el voto en euskadi vamos a verlo señor gatzagaetxeberria no se preocupe nosotros no tenemos cien años de historia

tenemos cinco somos humildes pero ahí están también los logros obtenidos

cinco diputados algunas encuestas nos dan en fin treinta cuarenta diputados

debería pactar seguramente con upyd en fin ya veremos a ver qué es lo que ocurre el partido nacionalista vasco seguiría con cinco seis siete diputados

por lo tanto dénos tiempo y no se preocupe porque igual en la próxima interpelación

en todo caso nosotros defendemos unos principios en los que creemos yo creo que la gran mayoría de la sociedad vasca y esto quiero decirlo también es

por supuestísimo que sí y ya sé que hay que cambiar la constitución española ya sé cómo funciona el sistema

pero nosotros lo proponemos en público y en abierto y pensamos que hay que cambiar esa serie de normas para conseguir

por qué los catalanes quieren ahora un sistema como este este sistema se puede ampliar al resto de comunidades autónomas señor gatzagaetxeberria o sumaría más de cien

es decir si todos los ciudadanos somos privilegiados en fin cómo se mantiene el sistema sumaria más de cien

es factible trasladar este sistema de concierto económico y el cálculo del cupo tal como está al resto de comunidades autónomas lógicamente no ya sé que las peculiaridades de los territorios históricos tienen encaje constitucional a día de hoy perfectamente pero nada en ello garantiza el derecho a disfrutar de los privilegios económicos derivados de la forma en que se ha calculado históricamente el cupo tales privilegios suponen una clara violación de la prohibición constitucional de que los regímenes autonómicos comporten en ningún caso privilegios económicos o sociales

el artículo ciento treinta y nueve punto uno proclama que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del estado

sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales es decir

sido una negociación política no un cálculo estricto lo que ha hecho ha sido provocar desigualdad y sobrefinanciación de unos ciudadanos frente a los restantes esto es una evidencia por lo tanto el cálculo del cupo

en fin el señor lópez lo decía hace escasos días el concierto no está en cuestión decía él pero hay que abordar una financiación solidaria claro

financiación solidaria por lo tanto nosotros proponemos en el corto plazo calcular bien el cupo para que aportemos realmente a la solidaridad del resto de los españoles cosa que no se hace a día de hoy y en segundo lugar efectivamente suprimir el concierto económico porque es

que exista este régimen en españa y en el conjunto de europa y no tiene ningún futuro eskerrik asko maneiro jauna jaurlaritzaren

más de la mitad de su intervención yo creo que igual

no voy a entrar a eso ya le he dicho que no le deseo buena aventura política

usted vuelve a insistir en algo que yo ya le he contradicho y que le he demostrado léase usted la jurisprudencia europea sobre el concierto económico régimen general perfectamente ajustado

política es decir entidad territorial dotada de estatuto político de autonomía

autonomía en la capacidad de decisión y de toma de acuerdos en materia de fiscalidad y tres autonomía económico financiera las decisiones que se toman en euskadi financiera en el plano tributario en lo financiero nunca pueden ser compensadas por el estado ni para lo bueno ni para lo malo son las reglas del juego

dotado y en el pacto entre instituciones vascas y las instituciones del estado si usted no entiende eso es que

de tratos favorables eso y segunda cuestión léase

que interpretan el bloque constitucional español no le estoy hablando

léase no hay infracción de la igualdad no hay infracción de la solidaridad no hay infracción de la prohibición de privilegios territoriales ninguna de ellas marco europeo marco español esas son las reglas del juego y cuando usted dice no es que euskadi no tiene solidaridad pero si ya se lo he explicado

euskadi supone el seis coma veintiuno por ciento del producto interior bruto de la economía española con los últimos datos

a estos efectos que es el ministerio de economía el índice de imputación

por debajo de lo que estamos aportando lo que está establecido

financiamos aquello que el estado desarrolla en competencias que no están asumidas por la comunidad autónoma de euskadi

y además de todo se lo vuelvo a repetir léase usted las cuentas no le voy a traer aquí a la tribuna

no las voy a mencionar que son perceptores

financiamos en función de lo que el estado dote el fondo de compensación interterritorial

si usted no entiende cómo funciona la solidaridad no puede decir que hay una infracción de la solidaridad se lo digo sin ninguna acritud

este es el funcionamiento y el concierto con el cupo hay que entenderlo como una unidad el concierto es la madre de la criatura y el cupo es una concreción

del cálculo como los mecanismos de compensaciones y ajustes están perfectamente detallados en la parte financiera del concierto económico lo que hace

es una concreción una concreción de la aplicación de un índice tanto en lo que se refiere al índice de imputación como al juego de las dos variables del índice de capacidad recaudatoria

y eso como comprenderá modestamente las instituciones vascas siempre tienen algo menos de información de lo que tiene la administración general del estado cuando las cortes aprueban estas cuestiones y estos índices esas son las reglas pactadas y

perfecto encaje futuro bueno en la unión europea y el concierto ha dado solidaridad estabilidad e igualdad y voy a terminar poniéndole un ejemplo euskadi es la única comunidad autónoma que en base

tiene un sistema complementario en la seguridad social lo que el conjunto de los españoles tiene el sistema público de la seguridad social a donde no llega la seguridad social española está el sistema vasco de garantía de ingresos que otorga ese estándar de protección en el que se configura el modelo de protección social vasco nada más y muchas gracias

de anteriores gobiernos y de este gobierno ha sido siempre claro en relación a este tema

este mismo miércoles hemos celebrado el consejo interdepartamental de emakunde una institución que estos diecisiete años ha mantenido siempre una nítida posición en relación a esta cuestión

me va a permitir usted señora etxeberria dar lectura a la siguiente declaración de esta institución de emakunde desde el inicio del conflicto de los alardes de hondarribia y de irun

en igualdad de las mujeres en los diferentes alardes de ambos municipios desde el gobierno vasco hemos acompañado a los alardes mixtos desde su creación hemos acompañado y hemos instado a las autoridades competentes a que adopten las medidas necesarias

en estos actos públicos y festivos las diferentes directoras de emakunde

les han brindado su colaboración para facilitar que las mujeres puedan desfilar en igualdad el gobierno vasco siempre ha defendido que los alardes tienen que garantizar el derecho de las mujeres a participar en ellos de forma igualitaria

la declaración que desde emakunde y por lo tanto desde el gobierno vasco consta y que espero que también usted pueda reconocer lo que ha sido la implicación de emakunde

tiene usted razón por lo tanto señora etxeberria el gobierno vasco no es ni ha sido nunca

esta es una cuestión que siempre ha suscitado preocupación en el seno del gobierno y bueno es reconocerlo en el seno también de todas las instituciones públicas usted

al ayuntamiento de irun al ayuntamiento de hondarribia cita al ararteko cita a emakunde en la interpelación por escrito no lo ha citado pero lo ha hecho usted aquí ahora de viva voz con una mención también a la diputación foral de gipuzkoa realiza también usted una mención expresa al departamento de seguridad del gobierno vasco que en este caso

justo y necesario decirle que no se ajusta a la realidad en absoluto pero creo que esto también obedece a una constante que espero que se vaya superando en

lo importante es que le confirmo que esta cuestión suscita preocupación en el seno de todas estas instituciones públicas también por lo tanto de la diputación foral de gipuzkoa me consta

pero que tampoco gobernada por bildu tampoco ha logrado resolver este tema a plena satisfacción señora etxeberria

no se imponen a la fuerza el pasado año por ejemplo la diputación foral de gipuzkoa emitió un comunicado en el que puso de manifiesto

tratar de contribuir a superar este escenario de confrontación y lograr resolver este conflicto

bien el gobierno vasco ha dado los primeros pasos para hacer algo distinto y le supongo a usted conocedora de los pasos que está dando con absoluta discreción este gobierno ha tomado la iniciativa en una línea de trabajo discreta y en contacto directo con los agentes locales directamente implicados hemos comenzado inicialmente en una de las dos localidades

y nuestra apuesta se resume en los siguientes objetivos a corto plazo buscar acuerdos básicos para que este año la celebración del alarde en el recinto propio se desarrolle en un clima de convivencia y respecto

para las siguientes ediciones del alarde trabajando directamente con los agentes locales directamente implicados esto es lo que estamos haciendo insisto

para generar una dinámica de apoyo interinstitucional que dé cobertura a los objetivos anteriores quiero reconocer

son modestos sí lo reconozco ahora bien incluso en estas circunstancias se está comprobando que su cumplimiento no es sencillo por muy modestos que sean si no lo conseguimos para este año seguiremos intentándolo en los siguientes con más pasos que hayamos podido ir dando en esa relación discreta que mantenemos